el comité europeo de derechos sociales en su último informe de enero de este año detecta violaciones específicas de la carta social europea en el estado

destaca el comité que la exclusión generalizada de las personas inmigrantes en situación irregular dentro del llamado sistema nacional de salud constituyen una violación a la protección de la salud ya que se les impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones el comité europeo afirma textualmente que la crisis no debería de tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos

por la carta añadiendo que los gobiernos tenemos la obligación de garantizar con efectividad los derechos de la carta social precisamente

más necesitan la protección por lo tanto aunque el periodo analizado por el comité abarca desde el año dos mil ocho al dos mil once

del sistema nacional de salud se aprobó en abril del dos mil doce el comité

la adopción de esas medidas e insta al gobierno de españa a corregirlas nosotros desde el primer momento mantuvimos que las medidas establecidas

rompen consensos sociales básicos en relación con las políticas de salud

pasar de un modelo de sanidad universal y sufragado a través de impuestos a un modelo

retrocediendo casi treinta años retroceso que como es evidente afecta más a los derechos básicos de las personas más frágiles pensionistas

inmigrantes mayores de veintiséis años que no han realizado todavía su primer trabajo

todo ello pretende desfigurar el sistema sanitario de euskadi basado desde los inicios en los principios de universalidad equidad solidaridad

osasun eredua eta horrela salatu dugu askotan nosotros al igual que el comité europeo

las competencias en materia de sanidad han supuesto en euskadi mejoras en salud calidad asistencial y bienestar para nuestros ciudadanos nos ha costado esfuerzo desarrollar nuestro sistema sanitario mantener su sostenibilidad y ganar la confianza de las vascas

el comité incluye en su informe que las prestaciones son inadecuadas en la mayoría de las comunidades autónomas haciendo una mención expresa

no tienen carácter vinculante pero sin duda constituyen una interpretación autorizada de primer nivel

por tanto el sector naval es desde luego estratégico para nosotros pero no solo por las cifras que le he ofrecido si no también porque presenta rasgos diferenciales que nos permiten estar ubicados

el gobierno vasco junto con el cluster del sector el foro marítimo constituyó un grupo de trabajo en el que hemos venido trabajando en cuatro áreas principales en un nuevo sistema

en aspectos de internacionalización dándoles un apoyo específico

trabajando en un sector como puede ser el eólico offshore donde se ven grandes oportunidades

y consorcios de empresas que les permitan ubicarse en ese ámbito internacional en esas líneas estamos trabajando considerando que es un sector estratégico y que tenemos que seguir apoyando

actuaría con visión nacional y es evidente que no lo están haciendo

significa construir una red de cooperación con todos los agentes implicados en la actividad para construir alianzas estratégicas que coadyuven a crear un sector fuerte

sea competitivo a nivel internacional la competitividad que ustedes predican no significa que los astilleros vascos tengan que competir entre sí para conseguir nuevos contratos todo lo contrario porque además ya sabemos cuál suele ser la primera opción de muchas empresas para ser más competitivas el gobierno vasco podría y debería ser el motor

o coordinación o como quieran ustedes llamarlos trabajo en común a nivel nacional para demostrar fortaleza a nivel internacional esa tiene que ser la idea

queda muy bonito que usted y su departamento definan programas de inversión de internacionalización programas de avales para estas empresas pero si no hay contratos cerrados si no hay buques que construir todas estos avales sin una definición y una apuesta clara por el sector no servirán de nada aplicar una visión real nacional en

por su parte actuar con responsabilidad y eso es lo que les pedimos

a los trabajadores y trabajadoras porque si alguien está actuando con responsabilidad en esta cuestión son todas esas personas actúan con responsabilidad luchando por mantener

una comarca con la mayor tasa de desempleo de euskal herria y con mayor precariedad

o que pretenden que se queden tranquilos en sus puestos de trabajo viendo como cada día pierden carga de trabajo y nadie hace nada por conseguir nueva carga de trabajo

de que un día la naval se cierra porque no hay carga de trabajo y nadie toma cartas en el asunto

ese día llegará no creo que haya que recordar que cuando el gobierno socialista privatizó la naval

se mostró totalmente en contra de la privatización hoy esperamos señora tapia que la entonces preocupación del actual lehendakari la haga suya

y se implique con la mayor determinación por hacer de la industria un sector naval y con futuro

y termino le pedimos implicación al gobierno vasco y solucionar este problema y
que no deje en el sector al albur de los caprichos capitalistas eskerrik asko

qué es el foro marítimo vasco sino un lugar donde se encuentran implicados

qué es el foro marítimo sino un lugar donde se coopera para conseguir nuevos contratos y nuevas actividades

toda la actividad internacional que se realiza no solo por los astilleros sino por el gobierno por todo el sector que por ejemplo cuando estuvo de visita la señora comisaría europea de innovación investigación y ciencia se presentó un proyecto concreto el proyecto marin el donde precisamente la naval está participando qué es eso sino

públicos y privados desde luego esa es nuestra vocación y nuestra actuación pero nosotros no efectuamos no llevamos a cabo ninguna política para una empresa la llevamos para todas las empresas del territorio todas son importantes para nosotros y tenemos una serie de medidas que todos ellos conocen y en este caso en el sector naval nos hemos implicado desde el primer día no tenga usted ni la menor duda eskerrik asko

a todo los trabajadores de la naval que están hoy aquí con nosotros consejera la respuesta anterior

la que le tengo que hacer porque usted habla en general y estamos hablando de una empresa concreta que sí es importante porque es estratégica en el sector naval porque afecta a la margen izquierda comarca castigada

tiene que implicarse directamente en la construcción de barcos a parte de proyectos particulares o tangenciales por eso le digo qué está haciendo el gobierno vasco para que ayudar a que la naval
tenga una carga de trabajo que le permita continuar su actividad de manera estable eskerri asko reyes jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

hori da gure estiloa beti izan dena no voy a repetir las políticas que para el propio sector naval están disponibles por parte del gobierno desarrollando junto con el propio sector haciendo frente a lo que ha sido el problema del tax lease y todavía no se ha solucionado del todo como comentaba

herramientas de acompañamiento a disposición de las empresas de forma personalizada en el trato pero común para todos no hay ni una empresa ni un trabajador más importante que otro en euskadi

su equipo y lo saben porque lo hemos trabajado de cerca y no de forma pasiva de forma activa lo que no se puede pretender es que como usted decía

no es nuestro objetivo ahora bien nos encontrarán así lo he entendido yo y perdóneme si no ha sido así pero así lo ha dicho que el gobierno vasco construya no es nuestro objetivo ni siquiera convertirnos en el departamento comercial ni de la naval ni de ninguna otra empresa ahora bien estaremos cerca

ayudando participando en todas las actividades que ellos vayan a llevar acabo y cada vez que nos lo soliciten como así lo hacen ahí nos van a encontrar siempre pero no somos el departamento comercial ni de la naval

participamos con todas con nuestras políticas de forma personalizada mila esker eskerrik asko tapia andrea reyes jauna zurea da hitza

evidentemente consejera yo no quiero que el gobierno construya barcos pero sí quiero que se ocupe de los problemas de todas y cada una de las industrias que los tienen específicamente es decir que

de financiación y eso significa que el gobierno tiene un margen de actuación que puede intermediar que puede poner en contacto que puede respaldar

no lo están haciendo usted está constantemente en los medios de comunicación que parece la jefa de prensa de los astilleros pero no es eso es la consejera de un gobierno que tiene que actuar no solo hablando con el foro marítimo sino implicándose directamente con discreción pero implicándose y buscando apoyos mire hay precedentes de actuación del gobierno en la pasada legislatura

en el extranjero se acompañó de miembros del foro marítimo de algunos por varios países y el gobierno ayudó decisivamente para la contratación de la última draga pregunte usted sino en el sector ustedes no han hecho esa labor habla y no actúa tiene que respaldar la actuación de la empresa por ejemplo parece que la naval ha firmado una carta de intenciones para construir un barco

la financiación pues mire ayudaría mucho que usted estableciera contactos con instituciones financieras con inversores para respaldar para intermediar algunos como kutxabank tienen relación

e invierta en la construcción de un barco por ejemplo o allegue a otros también podría usted explorar

o con fórmulas de capital riesgo porque la participación

ayudaría a orientar las posiciones de los socios en la misma dirección

que ni se le ocurre usted habla en un foro y sale en la prensa se acabó eso es lo que está haciendo este gobierno o por qué no ha puesto usted a trabajar la red internacional de la spri silenciosamente pero a trabajar

el sector lo sabría necesariamente y dicen que no o por qué no usa usted un instrumento que fue fecundo con el gobierno socialista para ayudar al sector naval

tiene que devolver dinero el que se estime no el astillero sino el inversor luego

condicionando la de otros astilleros ese no es el problema principal por ser un problema sin embargo lo que no ayuda

eso sí espanta a los posibles inversores hablar de la devolución del dinero si no actúa usted discretamente para ayudar sea usted discreta para no perjudicar consejera y un consejo apóyese también en los sindicatos

en cualquier caso como el gobierno no actúa concretamente los socialistas seguiremos haciendo una ofensiva en las instituciones para ayudar a salvar

señor reyes me habla usted respaldar cooperar discretamente bueno precisamente eso es lo que estamos haciendo

hablando precisamente con la parte inversora y la parte financiadora y eso es en lo que estamos trabajando no hoy sino desde hace mucho tiempo

la fórmula concreta y exacta para conseguir contratos es difícil es una combinación complicada con muchas variables e innumerables factores pero desde luego

generando el mínimo de incertidumbre posible y usted me decía

es a la naval al único que tiene en este momento un problema con uno de sus inversores

el gobierno anterior hizo muchas cosas hay una que desde luego le voy a decir de aquellos polvos estos lodos y precisamente el señor almunia

y desde luego creo que todavía militante del partido socialista

para conseguir que el resultado de lo que fue en julio del año pasado hubiera sido otra cosa eso hubiera sido importante para el astillero hoy en día aun así nosotros seguiremos trabajando para que

y que continuemos teniendo carga de trabajo como ha sido hasta ahora eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

buenos días lehendakari buenos días señor erkoreka hace casi un año

regulador de la justicia gratuita aprobado en la anterior legislatura defectos importantes que llevaron a los colegios profesionales a tener que tomar medidas de presión usted aunque no nos detalló cómo ni en qué plazos

pero lo cierto es que aunque se ha avanzado aunque se han hecho cosas sin embargo muchos de los problemas que yo relaté aquí

siguen existiendo problemas en la tramitación y así lo reconocen los colegios

que se han realizado por parte de los profesionales y que no se han cobrado y como he dicho aquí compartirá conmigo señor consejero

esa labor realizada esto ha dado lugar a la toma de medidas por parte de los colegios ya que incluso el ararteko tuviese que intervenir por ello

no acaba de dar una solución definitiva a los problemas generados por la anterior regulación dando cumplimiento además a lo aprobado en esta cámara y a lo comprometido por usted corrección para que el servicio

vendría de la mano de la redacción de un nuevo decreto que diera seguridad a los profesionales

en la defensa y no en la tramitación del expediente y que garantizase que quien trabaja cobre por ello por ello señor erkoreka cómo está trabajando su departamento para soluciones estos problemas va a llevar a cabo una nueva regulación

y si es así va a contar con los abogados con los profesionales y es lo que va a plantearles en la reunión que tendrá con ellos próximamente que aunque cuando presentamos esta pregunta
no había fecha fijada ahora ya sí que la hay muchas gracias y espero su respuesta eskerrik asko llanos andrea erantzuteko gobernuaren ordezkaria den erkoreka jauna zurea da hitza

cuando usted afirma que efectivamente el gobierno anterior aprobó un decreto sobre la justicia gratuita que resultó objetivamente lesiva para los intereses de los colegios de abogados y estos reaccionaron

y cuando recuerda que hace aproximadamente un año aquí efectivamente se aprobó una

no puedo compartir la valoración negativa que hace usted de la actuación del gobierno durante este año porque mire le voy a relatar primero qué es lo que hemos hecho y después si quiere entramos en las valoraciones sobre eso

con los colegios de abogados que estaba literalmente roto al término de la pasada legislatura en segundo lugar hemos pactado con ellos

y mientras tanto trabajar para descargar la excesiva carga documental que contemplaban sus anexos en relación con las exigencias que se planteaban para los

en tercer lugar hemos comprometido también con los colegios de abogados que las comisiones de asistencia jurídica gratuita van a por un lado revisar los autos de insolvencia algo que venía reivindicando de tiempo atrás y en segundo lugar vamos a simplificar los procedimientos de solicitud de la justicia gratuita en relación con las personas que son receptoras de la renta de garantía de ingresos lo cual simplifica

y en último término un logro histórico hemos facilitado el acuerdo entre los colegios de abogados y las diputaciones forales para que las oficinas de asistencia jurídica puedanacceder directamente a través de los mecanismos tecnológicos establecidos telemáticamente a los

son reivindicaciones todas ellas importantes aligeran los problemas que planteó el decreto anterior y están todos pactados

señora presidenta señor erkoreka o los abogados son unos inconformistas absolutos y por sistema

no lo tienen tan claro es verdad que ustedes les han anunciado la modificación de la redacción de un nuevo decreto pero no les han dicho que ese decreto está ultimado

que probablemente tendrán el once de marzo creo que en parte es una reunión que se va a realizar para eso yo me alegro de que se avance es verdad que la situación era una situación absolutamente

incomprensible que quien se tiene que dedicar a prestar el servicio

trámites administrativos porque evidentemente eso perjudicaba considerablemente el servicio prestado a los ciudadanos yo espero que se dé una solución definitiva porque es cierto que

pero los profesionales lo que exigen es que eso aparezca recogido que eso aparezca regulado para que de esa manera tengan una seguridad jurídica que siempre va a suceder así y que no va a depender de la voluntad del gobierno de turno

público porque aunque sea prestado por profesionales no olvidemos que se trata de un servicio público hablar es fácil y actuar es más complicado pero como se dijo aquí se trata de un servicio público

que tiene una gran relevancia y que por lo tanto a qué están esperando para regularlo

el retraso del decreto tiene una justificación clarísima el retraso ya secular de la ley que tiene prometido el gobierno central en el ámbito de la justicia gratuita sí sí es que hace año y medio que lo tienen metido en el cajón ese sí

y ahora le hablo de la valoración que están haciendo los colegios de abogados fíjese usted que se nutre mucho de la prensa para hacer sus iniciativas entrevista

en cuanto toma posesión le preguntan cómo son las relaciones del colegio con el departamento de justicia del gobierno vasco

también entiendo que el colegio pide las cosas que tiene que pedir y el departamento nos da lo que pide

este mismo mes el doce de febrero el colegio

una circular a todos los colegiados que concluía después de describir todo lo que están llevando a cabo y yo acabo de citarle en mi primera intervención decía esto sí es trabajar y apostar decididamente por el derecho de asistencia jurídica gratuita no lo digo yo lo dice el decano y la junta del gobierno del colegio de abogados de bizkaia

pero no me diga que no hemos hecho nada y por supuesto no oculte el problema de fondo que es la falta de una ley de justicia gratuita prometida por el gobierno central desde hace ya mucho tiempo ayúdeme a conseguirla en serio usted que tiene buena relación con rajoy señora presidenta

gracias presidenta buenos días a todos señor lehendakari creo que

otro error grave en la larga lista de errores cometidos por este gobierno en lo que se refiere a la lucha contra eta

que están dispuestos a entablar un diálogo

el señor erkoreka es un gravísimo error y espero que nos lo reconozcan y si no es así nos lo aclaren porque así lo entendimos todos y así lo recibieron los medios de comunicación y así pudimos escucharle a usted señor erkoreka

en primera instancia dijeron en todo caso y puesto que ustedes han mostrado esa voluntad quería preguntarle si están dispuestos a

hablar con la autoridad judicial competente para avisar

para proceder a detener a los delincuentes y a los terroristas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

señor maneiro lo que he manifestado y lo que ha manifestado el gobierno vasco es que vamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para lograr un final ordenado de eta esto es lo importante

y no voy a participar de conjeturas o especulaciones que nos distraigan de lo importante

sí le quiero recordar que todos los gobiernos democráticos españoles todos han entablado un diálogo con eta directo y o indirecto ninguno de estos gobiernos democráticos ya fuera presidido por suárez calvo sotelo gonzález

ninguno hasta el presente ha comunicado el lugar y la hora a los cuerpos de seguridad del estado que yo sepa y si lo hicieron el resultado es que los en aquel momento interlocutores

también quiero recordarle que todos estos contactos y diálogos tuvieron lugar cuando eta atentaba ahora no lo hace ahora nos encontramos ante la oportunidad del final ordenado de eta se ha producido el cese definitivo de la acción armada

se ha iniciado otro momento que llevará al desarme completo de eta espero que desde hoy sea también constatable este paso va a conducir a la disolución definitiva de eta y la sociedad vasca espera que esta disolución

lehendakari hablemos claro usted dice vamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan descartan ustedes cualquier tipo de contacto en cualquier caso puede responder sí o no por favor están dispuestos a contactar porque esto fue lo que dijo el gobierno vasco la semana pasada y evidentemente

ha sido una gravísima equivocación y un pasó atrás en la lucha contra eta y nuestra

que no vuelva por esa senda y que no plantee cosa parecida porque de lo contrario usted está legitimando a eta no hay nada que dialogar con eta

circunstancia lo que hay que hacer es aplicar la legislación vigente

esto es lo que hay que hacer detener a los delincuentes hacer justicia

no hay puentes que tender como decía ayer marlaska

no hay puentes que tender los puentes son las leyes y por lo tanto la obligación de los gobiernos es hacer cumplir las leyes y les pedimos que no

enreden al resto a través de ese tipo de

nadie tampoco nos enreden determinados figurantes que se llaman a sí mismos verificadores hablemos claro hablemos claro hoy mismo hemos asistido al último cinismo político de los miembros y representantes de que tienen la poca vergüenza de asistir a un homenaje a buesa y a casas sin haber condenado a eta eso es engañar a la sociedad

a enredar y usted tiene que decir que no se va a dejar enredar ni por aquellos ni por ningún otro por nadie aplicación por lo tanto de la legislación vigente eso es lo que pedimos defensa del estado comprométase usted hoy aquí en sede parlamentaria comprométase a no dialogar en ningún caso con la banda terrorista

dígalo claramente es lo que le pedimos un mensaje claro en ningún caso van a hablar

circunstancia es lo que nosotros le pedimos no se enreden no nos enreden al resto

objetivo por lo tanto derrota definitiva e incondicional de la banda terrorista eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jaunak dauka hitza

yo no voy a participar en el regate en corto y en el oportunismo ahora estamos señor maneiro en la construcción de la convivencia en euskadi

y la realidad ha cambiado y no tiene vuelta atrás y yo le pido que lo asuma y este principio de realidad evita inercias que nos devuelvan

y le pido que usted también viva de acuerdo a esta nueva realidad señor maneiro nosotros hemos asumido una responsabilidad con carácter integral trabajamos en el marco del plan de paz y convivencia para clarificar el pasado no podemos construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado trabajamos también

y trabajamos para garantizar una convivencia democrática y conciliada en el futuro señor maneiro

y para finalizar y respondiéndole señor maneiro quiero recordarle

la presidenta de su partido fue consejera del gobierno vasco del pacto de ajuria enea en el punto diez de ese pacto se dice

fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del estado y quiénes decidan abandonar la violencia no es fácil entender que alguien apoye el diálogo cuando eta atentaba

quizá la presidenta de su partido se lo pueda explicar a usted eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa bixen

hablar de la necesidad del diálogo social le ha costado más de un año ha incumplido reiteradamente en este tiempo un mandato parlamentario que los socialistas alentamos en esta cámara y al parecer porque su gobierno ha dicho que no parece posible que parece

pero en fin hace unos días y en declaraciones a un medio de comunicación usted aseguró que este año sí que este año el gobierno que preside se va a esforzar en impulsar el diálogo con los agentes sociales y nosotros queremos que hoy nos concrete en este parlamento cómo quiere impulsarlo

cómo pretende implicarse en un diálogo social que es además de un mandato parlamentario y una exigencia del acuerdo sobre empleo y reactivación económica que usted firmó con el partido socialista es además una obligación propia de la situación dramática en la que nos encontramos queremos que explique cómo quiere hacer realidad un principiocompartido que figuraba en aquel acuerdo

implican que el empleo sea una exigencia del conjunto de la sociedad vasca

también un compromiso de los agentes económicos y sociales una afirmación de principios

adorno retórico o una cláusula de estilo cuando se incluye entre las líneas de actuación del acuerdo un impulso por parte del gobierno vasco de las iniciativas necesarias al objeto de que patronal y sindicatos alcancen acuerdos sobre la negociación colectiva en euskadi

es hora ya de empezar a cumplir con los compromisos su gobierno ha aprobado ya el programa marco por el empleo y la reactivación económica fruto del acuerdo que firmamos en septiembre

para avales y ayudas que necesitan las empresas vascas para seguir creciendo pero nos preocupa enormemente la incapacidad de su gobierno para socializar este conjunto de medidas

nos preocupa que este programa para el empleo haya recibido la misma respuesta social que el que recibió ese mini plan de empleo

y que recibió un fuerte tirón de orejas del consejo económico y social y nos preocupa sobre todo que esta ausencia de pedagogía social se siga manteniendo cuando mejores condiciones hay para ejercerla porque han cambiado de arriba a abajo las condiciones en que se inició la presente legislatura han cambiado los objetivos las prioridades y los criterios la agenda política en suma con la que usted inició su mandato nos preocupa en definitiva

y en medio de unas relaciones sociolaborales tan marcadas por el desencuentro entre sindicatos y empresarios su gobierno continúe desaparecido y siga sin tener nada que decir a los agentes sociales ni siquiera cuando los socialistas le hemos puesto en las manos un programa sociolaboral para toda la legislatura y es perfectamente comprensible señor lehendakari

prolongando la experiencia sumamente positiva de la anterior etapa socialista

era difícil explicar a los agentes sociales que iban a aplicar en euskadi las mismas políticas de austeridad a ultranza que ya estaba aplicando el gobierno de rajoy y con los mismos criterios era difícil convocar una mesa de diálogo social para decir a los interlocutores que iban a aplicar un tajo de más

que recortaban en más de la mitad el programa de empleo en un tercio el de la vivienda o en una quinta parte los destinados a servicios sociales hablamos del primer presupuesto

entendemos perfectamente que convocar a sindicatos y empresarios para explicarles cuáles iban a ser sus primeros presupuestos

por eso tenía su lógica que ustedes miraran para otro lado mientras iba deteriorando la situación del empleo la reforma laboral introducida por el gobierno de rajoy hacía sus estragos en este país y las relaciones laborales se iban enrareciendo abocando más de trescientos mil trabajadores vascos a una total inseguridad jurídica

cuando su gobierno ha comprendido al menos sobre el papel que las políticas de austeridad agresivas son inviables

de edificar en este país cuando usted y su gobierno

la necesidad de poner en marcha políticas anticíclicas y de apostar decididamente por la incentivación de la economía y de la creación de empleo

y hoy pueden presentar a sindicatos y empresarios otra hoja de ruta que haga posible seguir implicando a ambos en nuevas políticas para combatir la crisis de manera conjunta que eso es lo que hizo el gobierno socialista desde el inicio mismo de su mandato

el primero netamente de izquierdas que ha tenido este país desde la aprobación del estatuto

que el acuerdo con los interlocutores sociales representa un elemento de equilibrio entre las fuerzas económicas y sociales que no debemos perder y entendió igualmente que la alternativa al diálogo social no es otra que la imposición pura y dura de los poderes económicos sobre los trabajadores

ya a oír mensajes inquietantes cuestionando directa o indirectamente la negociación colectiva y quiero recordar además que aquel diálogo fue fructífero y hizo posibles acuerdos importantes que estuvieron en la base de las grandes medidas económicas y sociales que se pusieron en marcha en la etapa anterior empezando por las medidas anticrisis el paquete de medidas más euskadi nueve que fueron aprobadas por ley al comienzo mismo de la legislatura

y creación de empleo medidas todas ellas de consolidación y reforzamiento de un modelo económico y social como el que los socialistas supimos defender cuando la crisis afectaba en dirección contraria y por eso reabrir el diálogo social ha sido una solicitud reiterada del grupo socialista desde el inicio de esta legislatura sorprendentemente todo lo que hemos recibido por respuestas a nuestros intentos ha sido un continuo dar largas

y eso es algo que no acabamos de entender no entendemos que lo que fue útil en un momento de crisis no lo sea

ni entendemos por qué los acuerdos sociales que fueron posibles con un gobierno socialista no lo pueden ser con uno del partido nacionalista vasco en cualquier caso lehendakari usted ha dicho hace

pero por eso queremos saber si es propósito de su gobierno impulsar las iniciativas que permitan concertar con otras administraciones y con los agentes económicos y sociales

y si para ello tienen intención de convocar la mesa de diálogo social con el fin de poner en común y articular más iniciativas con los agentes que acepten comprometerse con esta tarea

señor itxaso respeto que permanentemente ustedes tengan que hacer un ejercicio de reivindicación de la etapa del gobierno socialista y también entiendo que usted quiera construir un relato pero hay otro relato que yo quiero también

estoy totalmente de acuerdo con usted en la necesidad de trabajar conjuntamente con otras administraciones y con los agentes económicos y sociales para garantizar la máxima eficacia y aplicación del programa marco por el empleo

hemos querido que este objetivo quede recogido expresamente en diferentes apartados del plan de empleo aprobado por el gobierno vasco el pasado día veintiocho de enero con lo que fue el previo acuerdo también entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi le citaré cuatro párrafos a modo de ejemplo

para desarrollarlo son precisas la complementariedad y la colaboración entre todas las instituciones vascas la cultura del diálogo y la concertación social debe contribuir decisivamente al mantenimiento del empleo es preciso promover la cooperación institucional y la colaboración público privada

y el plan de empleo es un plan flexible y abierto que supone un compromiso de concertación política e institucional y estar alineado con los compromisos de otros agentes esta filosofía señor itxaso y el compromiso de concertación son evidentes

desde el primer día de andadura de este gobierno pese al relato que usted ha contado aquí hemos demostrado con hechos esta voluntad de concertación y acuerdo porque el programa el programa marco que aprobamos hace tres semanas tiene sus antecedentes

el día dieciocho de marzo de dos mil trece hace ahora once meses el que usted ha denominado mini plan desde aquel momento el gobierno vasco demostró su voluntad de concertación

abierto a las aportaciones de otras instituciones y de los agentes económicos y sociales señor itxaso el mismo día dieciocho de marzo envié personalmente

a los máximos responsables de los sindicatos más representativos

en la carta les solicitaba sus opiniones y aportaciones al plan de choque por el empleo

este mismo año ha incorporado las aportaciones recibidas respondiendo al objetivo de alinearse con el compromiso político institucional y económico social

quedó demostrado también con la convocatoria de la mesa interinstitucional para la reactivación económica y el empleo que se reunió el pasado ocho de mayo del año pasado

un encuentro de trabajo que compartimos con los tres diputados generales y la presidenta de eudel en representación de los ayuntamientos vascos

y comarcales de empleo así como activar de forma compartida proyectos de inversión pública dinamizadores de empleo fruto de este encuentro

institucional para la reactivación económica que ha permitido la puesta en marcha de inversiones públicas en los tres territorios por importe de ciento ochenta millónes de euros

el día doce de septiembre con el gobierno español para fijar los límites de déficit y endeudamiento para los ejercicios

además con las diputaciones forales hemos firmado también un acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de un sistema vasco de emprendimiento

se han aprobado y puesto en marcha diferentes proyectos municipales para impulsar planes locales de empleo esta misma semana se ha presentado el acuerdo concertado en donostia con la participación de cuatro instituciones públicas hemos propiciado también el entendimiento político el día veintiuno de mayo del pasado año

también a esto se debía aquella reunión en aquella reunión compartimos un diagnóstico de situación y propusimos a todos los partidos

cuatro de aquellos cinco consensos propuestos han fructificado el quinto está en camino y nuestro compromiso es poder alcanzarlo este mismo año el fruto

en el acuerdo suscrito el pasado dieciséis de septiembre entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco y el gobierno al que usted ha hecho referencia

una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva precisamente el programa marco por el empleo y la reactivación económica

para estos tres próximos años es uno de los ejes fundamentales de este acuerdo en este camino señor itxaso hemos demostrado también capacidad de concertación público privada así podemos recordar la firma de sendos convenios

para poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas líneas de financiación y avales por un importe total de seiscientos millónes de euros y como ejemplo también las catorce líneas de acción definidas para fortalecer la competitividad industrial

la nueva estrategia de formación profesional o el impulso a la internacionalización de la empresa vasca el fruto del compromiso con los agentes económicos y sociales

el pasado día veintitrés de diciembre recibimos el documento con las veinticinco recomendaciones al plan de empleo realizadas por el consejo económico y social órgano en el que están representados los sindicatos y las asociaciones empresariales

e incorporadas al plan aprobado el pasado día veintiocho como el propio consejo económico y social ha dicho ha manifestado en la comisión parlamentaria correspondiente días atrás

y conoce la iniciativa que adoptó el gobierno vasco a través del consejo de relaciones laborales los días cuatro y cinco de julio del año pasado

después de todas las que habíamos mantenido en privado con asociaciones empresariales y con sindicatos mantuvimos una serie de reuniones de trabajo ante el fin

no fue y lo sabe usted por falta de esfuerzo y compromiso del gobierno hemos demostrado por lo tanto una voluntad y un compromiso claro con la concertación
y el acuerdo que vamos a mantener en el tiempo se lo aseguro eskerrik asko lehendakari jauna jarraian itxaso jaunak dauka hitza

muchas gracias lehendakari por sus explicaciones comprenderá usted

para plantear las cosas si cuando en un momento dado el tema de debate da como contrargumento que no lo hicimos cuando estábamos en el gobierno y ahora cuando planteamos cosas que sí hicimos cuando estábamos en el gobierno se nos plantea

pues es que es prácticamente como una inhabilitación para todo nosotros hacíamos eso el gobierno socialista impulsó el diálogo social habiendo las mismas dificultades

entre otras cuestiones que han podido ser corregidas una de las tachas que ponía más importante al plan

la ausencia precisamente de intervención de los agentes económicos y sociales usted no ignora la importancia que tiene la concertación social

y máxime en los tiempos que estamos viviendo sabe realmente que el diálogo y la concertación social siendo importantes en todo momento

con el fin de la ultractividad con todos los aspectos negativos de la reforma laboral esto se hace más preciso que nunca y aunque esté sobrevolando sobre el espacio las reuniones que ha llevado a cabo el gobierno forman parte de su trabajo en fin damos por supuesto

y esperamos que den sus frutos pero lo que es nuclear lo que planteamos nosotros para llevar a cabo este acuerdo por el empleo y la reactivación económica necesita necesariamente

de los agentes económicos y sociales para darle la pátina de legitimidad para que sea realmente algo concertado algo con lo que realmente se pueda llevar a cabo todo esto

y luego por otra parte señor lehendakari nosotros tomamos la palabra pero es que los antecedentes que

en nuestra historia reciente no nos acompañan para digamos fortalecer esa credibilidad en este tiempo de legislatura hemos debatido estas cuestiones y de alguna manera se ha hablado de las dificultades que sí que no pero lo cierto es que a día de hoy ese objetivo

y sabemos todos lo sabemos estemos de acuerdo o no con esas estrategias sindicales que todo eso obedece a una actitud legítima por otra parte pero que bloquea este objetivo y esta misión

es que además de ideas hace falta también voluntad donde hay voluntad hay un camino y que usted puede emprenderlo por otra parte no me quiero remitir a los tiempos antiguos pero en periodos anteriores de gobiernos nacionalistas

fundamentales en el ejercicio de la inteligencia recordar todo eso

es que necesitamos algo más que palabras y algo más que una agenda cargada de reuniones queremos objetivos queremos ver que realmente hay un impulso y que está por encima incluso

legítimos pero que conturban esta cuestión tan importante y tan prioritaria

para llevar a cabo este acuerdo y todo lo demás

todas las cuestiones que serían largo y prolijo explicar usted lo sabe por eso

a que aquellas cuestiones aquellos planteamientos

que impidan llevar a cabo eso o que pretendan impedir llevar a cabo

los orille usted y vaya adelante con toda decisión nada más eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

con sumo agrado lo hago y lo reconozco

en la vía de la concertación lo que ocurre es que tanto en lo que es la concertación institucional como también lo que pueda ser el diálogo con los agentes sociales y económicos

voluntad del gobierno vasco es necesaria también la voluntad de la otra o de las otras partes y desde luego que desde el gobierno vasco orillamos lo que puedan ser los obstáculos pretendidos que puedan ser en una disputa legítima entre lo que puedan ser algunos de los agentes sociales y económicos

conscientes de la necesidad de incorporar por ejemplo en el desarrollo de las diferentes iniciativas del plan de empleo a cuantas instituciones y agentes económicos sea preciso y deseen hacerlo tengo muy presente una idea que expuse ante esta cámara

y dije que nuestro primer compromiso se centra en lo prioritario que es en la reactivación económica la recuperación del crecimiento y el empleo sigue siendo mi compromiso

del conjunto de las instituciones públicas y también

de los agentes económicos y sociales lo cual debería predisponernos a todas y a todos a la colaboración y a la concertación desde luego

la predisposición y actuación del gobierno es absoluta

no voy a entrar porque creo pese a lo que usted ha dicho que eran diferentes incluso en lo que ha sido las jornadas que tuvimos los cuatro y cinco de julio en relación a lo que pueda ser también una de las actuaciones de algunas de las partes de esos agentes sociales

el diálogo social es importante sin duda de hecho recuperar los cimientos de esta mesa de diálogo es un objetivo del gobierno para el presente año lo ha dicho usted en la primera intervención

nos obliga como gobierno ha seguir actuando el plan de empleo es ante todo un plan de acción y tenemos la obligación así lo siento yo tenemos la responsabilidad de continuar caminando

su complicidad y la corresponsabilidad así lo hemos hecho el día once de este mismo mes por referirme también a un último dato con las tres diputaciones forales aprobando un plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora

para impulsar los programas relacionados con la denominada garantía juvenil y la gestión de los fondos que le corresponden a euskadi de los programas europeos así vamos a hacerlo también con los agentes económicos y sociales como el mismo plan indica

con el fin de contrastar y compartir el seguimiento y ejecución del plan de empleo con el objetivo de ir transformándolo y mejorándolo fruto de esta evaluación conjunta además esta semana hemos conocido también por los medios de comunicación el reconocimiento de conversaciones entre los sindicatos y el gobierno la concertación

de nuestra política el diálogo social señor itxaso es un elemento esencial sí es necesario favorecer las condiciones para el desarrollo de acuerdos laborales que tengan como principal objetivo generar estabilidad en la empresa el pasado año casi la mitad de las empresas vascas cerraron el ejercicio sin acceder a beneficios

han realizado un gran esfuerzo para mantener la persiana abierta y para mantener el empleo y a estos efectos desde el gobierno vasco reiteramos que seguiremos teniendo las puertas abiertas para impulsar el diálogo y la concertación social

y contaremos en nuestro camino con los agentes económicos y sociales que deseen acompañarnos y trabajaremos para ello también y en este sentido está garantizada su presencia

la concertación social concluyo señor itxaso favorece la confianza necesaria para el mantenimiento de la actividad y el empleo para la inversión

oportunidades y en este objetivo siempre estará comprometido el gobierno vasco eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí muchas gracias presidenta señor lehendakari le pregunto por

público de vivienda que gestiona alokabide y las posibles modificaciones que se puedan introducir en la misma y en el resto

para tratar de perfeccionarla y acabar con determinadas injusticias que se han venido produciendo en los últimos tiempos y que han sido también planteadas y solicitadas por algunas asociaciones y por los mismos beneficiarios y usuarios de estas viviendas

oficial parece ser que el gobierno está elaborando una nueva orden con la intención de que esta nueva orden pueda tener efectos retroactivos a uno de enero

en fin queremos preguntarle por su contenido cuáles son los aspectos y cambios que piensan ustedes introducir en esa orden

esos cambios cuáles de las reivindicaciones de los inquilinos van a ser aceptadas cuáles

razonables cuáles consideran ustedes que no son razonables y que no pueden ser aceptadas la viceconsejera se debió reunir con plataformas y ciudadanos

cuál es la opinión del gobierno en relación a este asunto y qué es lo que piensa

quería preguntarle por lo tanto y quería plantearle algunas preguntas alokabide ha llegado a poner en marcha procedimientos de desahucio en caso de que se hayan puesto en marcha van a paralizarlos el gobierno va a intentar paralizar

podido poner en marcha van a dejar sin efecto las demandas judiciales sobre desahucios de alokabide en qué casos van a facilitar una más ágil revisión de los ingresos de los beneficiarios para revisar igualmente evidentemente a la baja la renta es decir reducir los plazos para poder revisar más rápidamente de forma más ágil en el corto plazo los ingresos de los beneficiarios para reducir a su vez cuanto antes

no superen el treinta por ciento de los ingresos de los inquilinos van a modificar estas cifras van a modificar estos límites en qué sentido

van a incluir las tasas y los gastos fijos de comunidad con la renta para que ese sumatorio digamos no supere el treinta por ciento de los ingresos del beneficiario es decir que se tenga en cuenta también los gastos fijos y las tasas que abonan estos inquilinos van a eximir van a proponer eximir del pago del ibi

oficial van a establecer mecanismos que permitan la participación directa de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad obviamente para poder reducir esos gastos que en muchos casos parece ser que son muy elevados

de algunas asociaciones y de algunos inquilinos que en nuestro caso pues efectivamente lo vemos como bastante razonable

en la gestión de los gastos de comunidad van a permitir que los inquilinos de alokabide puedan acceder a la ayuda económica complementaria de vivienda que concede el gobierno vasco

la revisión del precio base de venta de las viviendas de protección oficial porque el valor de los inmuebles se ha desvalorizado drásticamente en los últimos años y es el precio que sirve para determinar la renta de alquiler plantean algún mecanismo de permuta piensan

de doce de diciembre en fin le pregunto por todo esto cuáles son las intenciones del gobierno qué es lo que ustedes consideran que puede ser aceptable

consideran ustedes que no es aceptable observamos en todo caso nosotros que en lo que se refiere a las viviendas de protección oficial

en todo caso hay margen para introducir mejoras y esperamos que el gobierno esté dispuesto a introducir determinadas mejoras de modo que puedan evitarse situaciones injustas y dramas personales y familiares incluido el desahucio

y los recortes sociales y la situación de incapacidad de pago sobrevenida que padecen algunas personas consecuencia de la situación de crisis económica por lo tanto algunas personas

piensa hacer qué es lo que cree que puede hacerse qué es lo que va a hacer en el futuro inmediato para corregir determinadas injusticias que se han venido produciendo en los últimos tiempos gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro el gobierno vasco

y actualización de la normativa de vivienda de protección oficial quiero comenzar por dejar claro que gracias a estas medidas hoy en día en euskadi contamos

primero la renta de alquiler no supera el treinta por ciento de los ingresos y segundo disponemos de mecanismos para evitar un desahucio

en euskadi el decreto treinta y nueve barra dos mil ocho de cuatro de marzo regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en euskadi establece el marco jurídico esencial y a través de diferentes órdenes se desarrollan los aspectos contenidos en el mismo una de estas órdenes de desarrollo es la orden del tres de noviembre de dos mil diez que usted ha mencionado que regula las

esta orden afecta tanto a los promotores públicos como a los promotores privados que destinan las viviendas de protección oficial al arrendamiento protegido hoy todos los arrendadores se encuentran obligados al cumplimiento de esta orden de precios del año dos mil diez y a su vez pueden exigir el pago de la renta máxima

que la orden determina pero en todo caso el propietario de la vivienda puede establecer también el cobro de una renta inferior

esto es precisamente lo que ha acordado el gobierno vasco en relación a las viviendas de su propio parque somos conscientes señor maneiro y comparto con usted

económico para ser un problema de carácter social atendiendo a este problema el gobierno vasco ha puesto ya en marcha dos líneas de actuación para tratar de paliar

y se los quiero explicar la primera actuación es la instrucción dos barra dos mil trece de doce de diciembre hace escasamente dos meses

de medidas excepcionales en el cálculo de las rentas del parque de vivienda gestionado por alokabide son medidas dirigidas a los arrendatarios que se encuentran

el objeto de esta instrucción es reducir la renta a pagar por aquellas personas cuyos ingresos hayan disminuido de manera significativa y permanente

temporal de las rentas las personas arrendatarias deberán cumplir los siguientes requisitos haber superado el plazo de seis meses desde la suscripción del contrato de arrendamiento

el treinta por ciento de sus ingresos actuales que la disminución no obedezca la obligación de reintegrar cualquier ayuda de las administraciones públicas encontrarse en situación de impago o en riesgo de incurrir en impago por circunstancias sobrevenidas acreditadas que no se hayan iniciado previamente acciones judiciales es decir más de seis rentas sin pagar ni se constaten otros incumplimientos contractuales como el uso inadecuado

u otra situación conflictiva la segunda actuación señor maneiro es la instrucción uno barra dos mil catorce de veinticuatro de enero hace mes y medio de la viceconsejera de vivienda sobre rentas de alquiler en el parque de viviendas del departamento de empleo y política sociales mediante la aplicación de esta instrucción ninguna renta de las viviendas del parque público

el treinta por ciento de los ingresos de la unidad convivencial esta medida se aplicará con carácter universal como consecuencia de esta instrucción queda totalmente garantizado que toda persona adjudicataria de una vivienda gestionada por el gobierno vasco

no pagará más del treinta por ciento de sus ingresos ponderados como renta como consecuencia de las dos actuaciones citadas

hipotético desahucio por una incapacidad de pagos sobrevenida como usted me preguntaba reitero lo importante porque quiero que quede claro que hoy en día en euskadi contamos con esta doble garantía la renta de alquiler no supera el treinta por ciento de los ingresos y no hay desahucio por incapacidad de pagos sobrevenido

el gobierno vasco va a adoptar dos medidas adicionales la primera la anunció el consejero de empleo y políticas sociales a quien envío hoy un saludo en su comparecencia en comisión en este parlamento el diecisiete de diciembre del dos mil trece así alokabide

que será esta sociedad pública la que abonará

de las viviendas de su propiedad la segunda medida modificará las cláusulas de los contratos de arrendamiento del programa asap

para que sean las personas propietarias quienes deban hacer frente al pago del referido impuesto al igual

una vez adoptadas estas dos medidas ninguna persona adjudicataria de una vivienda del parque público en arrendamiento ninguna abonará el impuesto de bienes inmuebles

el gobierno vasco trabaja para flexibilizar y favorecer la rotación hacia otro tipo de vivienda

y en función de nuestras posibilidades este objetivo está recogido en el plan director de vivienda dos mil trece dos mil dieciséis y su aplicación será progresiva

y en relación también a los gastos de comunidad estos son abonados por las personas inquilinas de viviendas de alokabide y del departamento de empleo y políticas sociales

y en relación a esta cuestión y a esta gestión de los gastos de la comunidad o de comunidad creo que es importante recordar que hoy en día

viviendas y por tanto cuatrocientos comunidades de propietarios aproximadamente en todo caso el gobierno vasco analizará el modelo a

y se estudiarán también las posibles mejoras a introducir

somos plenamente conscientes de la situación por la que están atravesando muchas de las personas inquilinas de las viviendas del parque público disponible

el departamento de empleo y políticas sociales ha adoptado ya las medidas expuestas y seguirá adoptando aquellas que sean necesarias insisto en función de sus posibilidades nuestra orientación señor maneiro es el compromiso social vamos a impulsar de manera decidida el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y vamos a favorecer

estamos además comprometidos con la aplicación de una gestión más eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios y del parque público de viviendas

usted ha respondido o ha intentado responder creo que a cada una de las preguntas que le hemos planteado y se lo agradecemos

asunto que nos preocupa mucho la situación de miles de personas que como consecuencia de la crisis una crisis que ellos digamos no ayudaron a

ciertamente preocupante y ahí están o deberían estar los poderes públicos para

articular todas las medidas que sean necesarias para paliar esas situaciones bien

nos ha señalado una serie de medidas que

aceptables creo que hay una que está por encima de todas que es la de evitar que ninguna persona beneficiaria de este tipo de vivienda pueda ser

esto es y debería ser prioritario para el gobierno desde diferentes colectivos se nos ha comunicado que algún desahucio

y que su reivindicación obviamente es que traigamos aquí este asunto para pedir al gobierno que estos desahucios no puedan

quizás debería usted ser más conciso en relación a la revisión de los ingresos de los beneficiarios de los inquilinos una revisión digamos más ágil en el menor corto espacio de tiempo posible para que

rápidamente pueda ser reducida y no nos vayamos en fin a los seis meses o al año creo que a esto no me ha respondido

hacer la revisión en el plazo más breve posible para reducir también cuanto antes cuanto antes la renta que pagan los beneficiarios

con efectos retroactivos en relación también a las tasas la posibilidad de que las tasas y los gastos fijos de comunidad

de ese sumatorio que abonan los inquilinos y que ese sumatorio no pueda estar por encima del treinta por ciento de sus ingresos

puede ser aceptable nosotros la consideramos que debería ser tenido en cuenta

efectivamente ya me ha contestado y quizás una aclaración le pido en relación a la participación directa de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad

puedan hacerlos ellos mismos porque son determinados gastos que ellos consideran que

del todo necesarios y creo que en ese caso también podría haber cierto margen de mejora permitir por lo tanto la participación directa de los inquilinos

de comunidad como ve esta posibilidad el gobierno es una reivindicación también de los inquilinos en fin por lo demás creo que me ha respondido a todo lo que le he planteado seguro que hay alguna posibilidad de mejora en relación por ejemplo a la instrucción

plantean determinadas correcciones a esta instrucción del pasado año determinadas correcciones determinadas medidas correctoras técnicas que irían en la dirección de facilitar la vida de estas personas en fin aquí no tengo toda la relación de las propuestas que ellos plantean pero algunas de ellas al menos son bastante razonables por lo tanto se han adoptado medidas creo que se pueden adoptar otras medidas

a cuáles son las actuaciones del gobierno en esta cuestión y un hecho absolutamente fundamental en nuestra opinión y es que las viviendas de protección pública siempre destinadas a aquellas personas que más las necesitan creo que esa es una política que debería ser prioritaria por parte del gobierno todas por cierto deberían ser

que peor lo están pasando comprender la situación económica que vivimos y comprender también la situación económica

políticas sociales ha adoptado ya medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis económica y a evitar que las dificultades de pago sobrevenidas pudieran finalizar

a este fin hemos adoptado insisto medidas concretas que estamos aplicando primera medida se tendrá en cuenta los ingresos que se acrediten en el momento de la solicitud de revisión los que se acrediten en el momento de solicitud de revisión de la renta y no los del ejercicio fiscal cerrado

rentas acordes a los nuevos ingresos de todas aquellas personas que hayan sufrido una disminución importante en sus fuentes de ingresos

segunda medida para el caso en que existan deudas pendientes de abono

un acuerdo de pago sí con alokabide y estos acuerdo ya se han suscrito con casi

la intención de llegar a acuerdos con los usuarios con dificultades de pago tercera medida las rentas de las viviendas del parque público del gobierno vasco tendrán como límite el treinta por ciento de los ingresos ponderados de las unidades convivenciales

existe una proporcionalidad entre la cantidad destinada al pago de alquiler y la renta disponible hoy existetambién una garantía para evitar una situación de desahucio y el gobierno vasco va a seguir adoptando medidas una línea de actuación es plantear la modificación de la orden de precios de dos mil diez

a fin de adecuar los precios establecidos a la realidad económica y de mercado actual tanto en lo que es en compra como también

evidentemente señor maneiro y ante lo que es el emplazamiento que usted hace siempre existe margen de mejora tanto en la gestión como en la normativa aplicable ahora bien

como solución para las elevadas rentas a las que debían

ciertos inquilinos por lo tanto debemos

la bajada paulatina de las rentas de las viviendas del parque público del gobierno vasco una bajada que será aún más evidente

instrucciones que ya han sido anteriormente expuestas y que seguiremos también mejorando para finalizar

la labor que viene desarrollando el departamento de empleo y políticas sociales a través de la sociedad pública alokabide en la gestión

una gestión que se realiza sin ningún tipo de ánimo de lucro como le gusta expresar a alguno de los grupos parlamentarios el único ánimo de alokabide es

esta sociedad pública a través de su área social está realizando un esfuerzo para gestionar y atender directamente todos y cada uno de los casos en los que se produce una dificultad de pago alokabide está haciendo un acompañamiento a las familias que se ven afectadas

está ofreciendo soluciones para facilitar que estas personas puedan mantener su vivienda a pesar de las dificultades para hacer

este gobierno señor maneiro tiene muy claro que es esencial el valor de la dignidad de las personas como fundamento del desarrollo de la política de vivienda adoptamos

adoptaremos las medidas para garantizar que todas las personas

el gobierno vasco realiza periódicamente los controles y el seguimiento preciso para garantizar que los niveles de radiación electromagnética se sitúen por debajo de los límites legales establecidos en su pregunta señor maeztu plantea usted o pone el acento en la resolución

y quiero decirle que para lo que pueda ser una respuesta más concreta

no existe un procedimiento de adhesión de hecho nadie en europa se ha adherido a una resolución dena den europar batzordeak

del tribunal supremo del diecisiete de noviembre del año dos mil nueve la jurisprudencia señala que los ayuntamientos tienen competencias para establecer en las ordenanzas municipales

entre otras se identifican competencias adicionales para establecer límites de emisión para fijar distancias de protección de determinadas zonas o competencia

el derecho a la instalación de los operadores en determinado momento circunstancia o lugar denok zuhurtziaz joka dezagun

zurea da hitza sí gracias presidenta ayer
del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi se aprobó la creación de una ponencia sobre autogobierno para la actualización del autogobierno como expresión de la voluntad política del pueblo vasco es una pena

creo que es interesante que pudiera estar dado que ayer el portavoz del grupo nacionalistas vascos insistió

en la reivindicación y la defensa del derecho a decidir yo le quiero preguntar lehendakari si han aparcado o no han aparcado

a decidir yo quería preguntarle sobre los límites y los cauces legales establecidos para una posible reforma

quería preguntarle directamente si entiende usted que el derecho

que defienden los nacionalistas eufemismo del derecho a la autodeterminación es una falacia esa es la pregunta directa si entiende esto usted

no solamente usted sino el conjunto del grupo parlamentario de los nacionalistas vascos si entienden ustedes creo que ya va siendo hora de que lo entiendan que el derecho a decidir
entendido por ustedes es una falacia gracias eskerrik asko

el derecho a decidir no es una falacia eskerrik asko

es una falacia y es absolutamente inviable su aplicación y por lo tanto cuanto antes y por el bien de todos sería interesante que ustedes lo reconocieran

públicamente porque no va a poder ser que se ejerza ese derecho a decidir que ustedes plantean en ningún caso mira los ciudadanos vascos

en virtud de nuestras competencias y en el marco de la ley los ciudadanos vascos decidimos cada vez que votamos pero el derecho a decidir parcelado que reivindica los nacionalistas es una falacia y no existe a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles lo entiende usted señor lehendakari es decir el modelo territorial del estado

el conjunto de los ciudadanos españoles el modelo territorial del estado lo decidimos el conjunto de los ciudadanos españoles el censo electoral no se puede fraccionar y la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles creo que son conceptos

son muy sencillos de entender y lo que es muy importante son innegociables por lo tanto

asúmalos cuanto antes por el bien de todos porque efectivamente el derecho a decidir que defienden ustedes y aquellos pues no se va a llevar a cabo en ningún caso y esto es lo importante no se va a llevar a cabo en ningún caso y evidentemente es una

por mucho que alguno rebuzne eskerrik asko

yo le voy a recordar que ayer este parlamento aprobó la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno y hace exactamente trescientos sesenta y cuatro días trescientos sesenta y cuatro el día veintidós de febrero del año pasado dos mil trece en un pleno de control

que los objetivos y proyectos políticos deben ser aclarados en sede parlamentaria para que la sociedad vasca los conozca me lo exigía este momento ya llegó llegó también ayer ha llegado y como le dije entonces los proyectos

no solo deben ser aclarados en sede parlamentaria deben ser además

y decididos usted ayer presentó su propuesta federalismo simétrico y cooperativo además de otras consideraciones que hizo

la propuesta de federalismo simétrico y cooperativo estoy seguro señor maneiro que usted no plantearía ningún problema esta decisión

no solicitaría el recurso previo al tribunal constitucional para el federalismo simétrico y cooperativo tenemos derecho a decidir

le importaría que solo se pronunciara la sociedad vasca si

el federalismo cooperativo que usted plantea si este parlamento decide lo que usted quiere estoy seguro señor maneiro por mucho que usted diga que no

puede adoptar otras decisiones otras decisiones a las que usted plantea y usted entonces no lo admite entonces no tenemos derecho a decidir no tenemos derecho a decidir usted pretende limitar la capacidad de este parlamento y de este pueblo

de qué derecho tenemos que decidir por ejemplo entre la monarquía parlamentaria o el federalismo simétrico y cooperativo me puede decir usted en virtud de qué derecho

y desde la democracia se puedan conseguir todos los objetivos políticos

lo que ustedes llaman pueblo español le pregunto existe pueblo vasco señor maneiro vivimos un nuevo tiempo si usted considera que el año dos mil catorce

o que el año mil novecientos ochenta y cuatro que nada ha cambiado en euskadi que no es preciso que tratemos de alumbrar un nuevo proyecto político para este país está usted en su derecho por mi parte

tengo confianza en que vamos a ser capaces de plantear un nuevo estatus político para el futuro de euskadi una propuesta que deberá ser acordada

respetada la sociedad vasca va a tener siempre la palabra o va a negar usted señor maneiro a este parlamento y a este pueblo la oportunidad de acordar la oportunidad de aprobar la oportunidad de desarrollar un nuevo estatus político los derechos no se llevan a cabo los derechos se ejercen en virtud de qué derecho puede tomar usted esa decisión

esaten du en primer lugar por su relevancia la necesidad de incrementar la inversión pública

del empleo público non dago hori enplegu planean jasota resulta ser una auténtica recopilación de políticas desarrolladas por distintos departamentos cuando un plan de empleo debe ser algo extraordinario que refuerce las políticas estructurales en esta materia erantzunean kritika hori ez da onartzen gomendio hori

ni su continuidad esan zuen y la falta de diálogo con los sindicatos es una laguna

porque un buen desarrollo del plan va a necesitar una interlocución directa con los agentes sociales y económicos hau bera

bazterrean utzita nominak aztertu nahi dituzu bakarrik la pregunta es se puede

solamente con las nóminas desatendiendo lo que es el empleo estructural lo que son las plantillas presupuestarias sí la respuesta es sí sí es lícito claro que es lo que pasa es que operar con

mucho más rigor requiere mucho más lealtad y honestidad con los datos con las informaciones porque las nóminas nos aproximan

no es la evolución del empleo público no es el empleo estructural se puede sí pero operando con mucho cuidado cuidado que por lo que veo no ha observado ni el sindicato lab ni tampoco la diputada arrondo cuando hace estas valoraciones aquí mire

claramente entre lo que es un puesto de trabajo y lo que son las nóminas de manera que un puesto de trabajo un mismo puesto de trabajo en un mismo mes

un puesto de trabajo cuyo titular a lo largo del mes coge una semana de vacaciones y coge una baja de otra semana el mismo puesto de trabajo generaría a lo largo de ese mes tres nóminas la nómina del titular

durante las vacaciones de una semana y la nómina del que le sustituye durante la baja de otra semana tres nóminas

en un mismo mes bien cuando se comparan las nóminas hay que tener mucho cuidado para no

y es importante por eso distinguir entre los meses que son cordillera y los meses que son valle

un mes cordillera es un mes en el que hay muchas incidencias de nómina

días libres coge vacaciones o incluso por incidencia de la gripe coge una baja

el mes de noviembre por ejemplo es el mes por antonomasia calificado como valle

vacaciones casi nadie coge vacaciones y las incidencias que justifican una baja por enfermedad suelen ser notablemente menores qué es lo que ha hecho

un mes expresamente elegido un mes cordillera con un mes valle y la conclusión es evidente

que en un mes valle como noviembre hay menos nóminas que en el mes de enero que es un mes cordillera

si hubiese operado con lealtad hubiese comparado dos meses cordillera y dos meses valle hubiese comparado el mes de enero de dos mil doce con el mes de enero de dos mil catorce

en enero de dos mil once hubo cuarenta y dos mil sesenta y tres nóminas en osakidetza que es la primera referencia

en otro mes cordillera en enero de dos mil catorce hubo

es decir un nueve coma cuarenta y tres por ciento más non dago enplegu publikoaren suntsipena

geure buruari tranpa egiten baldin badiogu bai si comparamos un mes cordillera con un mes expresamente elegido además

es evidente que el resultado tiene que ser el que le ha salido a usted que hay menos nóminas en noviembre que en enero claro que las hay claro que las hay porque las incidencias de la nómina son siempre menores porque hay menos vacaciones y hay menos incidencia de las gripes y de las enfermedades que justifican menos bajas por ese motivo pero si compara usted meses homogéneos meses cordillera entre sí o meses valle entre sí lógicamente el resultado es completamente distinto

incluso en la nómina más grotesca todavía es la manipulación en el caso de la administración general porque claro se nos compara el mes de enero de dos mil doce con el mes de noviembre de dos mil trece claro es que la nómina en noviembre de dos mil trece era inferior a la de enero de dos mil doce entre otras cosas

treinta y cinco altos cargos menos y veintidós asesores menos fruto de la reducción de la estructura política de los altos cargos y del personal eventual que adoptó este gobierno desde un principio una reducción del veinte por ciento que aparece reflejada en la nómina claro ese veinte por ciento de más de altos cargos y personal eventual está recogido en la nómina de enero de dos mil doce que eran los altos cargos y el personal eventual del gobierno de patxi lópez

desaparecido como consecuencia de un compromiso efectivo real de este gobierno por la reducción de las estructuras políticas no aparece recogido en la nómina de noviembre

de empleo público eso en todo caso es fruto de un compromiso por la reducción de estructuras públicas honek guztiak erakusten ematen du

el catorce por ciento de las empleadas de hogar inmigrantes carece de papeles en bizkaia cincuenta y siete coma veintiséis por ciento de las trabajadoras autóctonas consultadas

el setenta y seis por ciento de las internas trabaja en dos mil trece más de sesenta horas que preveía como máximo

de sesenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho puestos a sesenta y ocho mil setecientos uno ehun eta hogeita hamairu más ez dago beraz

presidenta supongo que será la consejera la que conteste porque

y por eso me dirigiré a usted en realidad se trata de que nos dé explicaciones

recientemente la hizo pública el partido nacionalista vasco en relación a que si

en el caso del aeropuerto de foronda se comprometían con su financiación para poder

esta financiación al ayuntamiento y a la diputación y teniendo en cuenta por ejemplo en el caso del país vasco que nosotros participamos en la política presupuestaria nos ha llamado la atención esto porque querríamos saber

están pensando qué es lo que quieren hacer porque días después a este anuncio del partido nacionalista vasco el portavoz del gobierno señor erkoreka

con el partido nacionalista vasco en esa propuesta política explíquenos un poco mejor

trasladaba lo que es el compromiso del gobierno desde el primer día manifestado que es la apuesta por los aeropuertos vascos la apuesta

de foronda y lo que venimos defendiendo en todos los foros y en todos los lugares tanto al grupo nacionalista en el congreso en el senado en el ayuntamiento de vitoria

en diversas contestaciones por escrito que yo le he hecho y que viene a decir que

aeropuerto con tres terminales que queremos ser parte de la gestión aeroportuaria de las terminales de este país y con ello y le leo

con los votos de los tres partidos del grupo juntero ezker batua de socialistas vascos eh bildu cuatro grupos y eaj pnv como usted bien sabe que dieron lugar

en el que se dice en su punto segundo que se comprometen a apoyar financieramente el aeropuerto de foronda con el fin de mantener abierta la instalación veinticuatro horas siempre que las instituciones vascas

con capacidad para el establecimiento de una política comercial efectiva para esta infraestructura aeroportuaria que cubra entre otros la asignación de franjas horarias o la determinación de las tasas eso es lo que estamos haciendo en eso estamos trabajando estamos reclamando la competencia estamos elaborando un plan de gestión un aeropuerto tres terminales y

con esta enmienda que se aprobó eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera me ha respondido con lo que ya es público y yo obviamente no le he preguntado por lo que ya es público le he preguntado por lo que no es público

con una forma de gestionar los aeropuertos y además quiere comprometerse con la financiación de ese aeropuerto para que pueda recuperar el hache veinticuatro y todos los servicios

obviamente el gobierno tiene que tener una hoja de ruta tiene que tener un plan tiene que saber esa gestión en qué términos se quiere producir tiene que saber también cuál es el coste de volver a poner

en qué cantidad se cifra y de dónde va a sacar esos recursos

tiene que saber también cuál es la parte la proporción los recursos que va a destinar el ayuntamiento de vitoria y la diputación foral de álava porque están también según su plan concernidas

decir desde la responsabilidad de un gobierno ante algo existente como es en la logística

yo financiaría y estaría dispuesto a recuperar unos determinados servicios

y además usted en este pregunta está dialogando con quien representa a un grupo político que está comprometido

porque efectivamente no hay una disposición económica a este respecto

señalado y además fíjese en qué momento hacemos esta reflexión en un momento en el que los trabajadores que suelen tener más razón que nadie cuando anuncian malas noticias

es que el hache veinticuatro que se ha convertido en el hache doce ya no sea ni el hache doce sino que los fines de semana se cierren las veinticuatro horas por lo tanto estamos ante

para que este aeropuerto vaya perdiendo recursos vaya perdiendo trabajadores vaya perdiendo servicios vaya perdiendo calidad como aeropuerto y cada vez que se anuncia

un paso hacía delante para ser más ofensivos y para ser más ambiciosos resulta que la realidad del aeropuerto va hacía atrás cada vez hay menos de todo y este es el problema entonces usted tiene que plantear como consejera del gobierno como consejera que representa un proyecto

porque tiene un coste y porque tiene una responsabilidad presupuestaria y de acción de su gobierno tiene que dar detalles más puntuales más concretos tenemos que saber en este parlamento queremos saber desde nuestro grupo parlamentario qué es lo que pretende hacer usted porque

es más casi todo lo que se está haciendo hasta ahora con el aeropuerto de foronda son cantos de sirena ya haremos ya haremos ya haremos se prometen cosas se da gran publicidad y luego se va más bien hacía atrás por lo tanto en fin sea más concreta en su explicación cuál

señor prieto yo soy concreta y sabe usted desde hace tiempo ya porque se lo hemos remitido en diversas ocasiones desde mi departamento

lo vamos a terminar en este primer semestre lo dije el otro día también y ahí estamos fijando las bases de las políticas a corto medio y largo plazo con los objetivos claros y en un escenario en que la cuota de participación del gobierno vasco sea mayor que la actual

y se lo voy a traer a esta cámara pero además también quiero remarcar

intentando que el ministerio de fomento no de algunos pasos que está dando o que ha dado todo esto viene del plan de eficiencia que no es nuevo es de agosto del dos mil doce y venía de bastante antes si consideramos todo el tiempo de elaboración

hace bastante tiempo ya se veían venir las consecuencias de la aplicación del plan y el anterior ejecutivo vasco no llevó ninguna acción ante el ministerio de fomento para que foronda

horario amputado nosotros desde el minuto uno nos hemos implicado con esta problemática estamos trabajando con el ministerio de fomento estamos exigiendo

estamos elaborando un plan de gestión para presentarle al ministerio y ustedes también tendrán cumplida cuenta de todo ello eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

es ley vigente y aproximadamente casi tres

desde que este parlamento acordó respaldar

como no hemos sabido nada en este tiempo es por ello y por el interés informativo que reviste esta pregunta no solo para la comunidad educativa sino para la sociedad

le pregunto qué plazos manejan ustedes en qué fecha presentará

sí señora consejera epe laburrean pero cuándo oiga

uno de tres meses que termina y que concluye el nueve de marzo y otro que permite tener

organizando unas comisiones bilaterales de cooperación he de recordarle que la lomce ni en forma ni en fondo acepta ninguna cláusula ninguna colaboración ni ninguna cooperación es decir la trayectoria de este gobierno con la que se ha venido manejando este gobierno ha sido de alta ambigüedad con respecto a la lomce

por no recordar aquí las claudicantes declaraciones del portavoz de su gobierno manifestando o expresando su voluntad o su confianza en poder añadir alguna cláusula que permitiera que la norma atenuara los rigores de su aplicación en la comunidad autónoma vasca lo cual

ciertamente declaraciones claudicantes desconocedoras de la gravedad de la educación que nos estábamos trayendo entre manos con la lomce y desde luego incapaces de tener el debido coraje para sostener y defender

el punto de encuentro es decir el estatuto de autonomía y la defensa de las competencias educativas por tanto era acuerdo con rajoy

que les sustenta con respecto a la reforma de la administración local algo inaceptable salvación individual

inaceptable ahora usted ya ha entrado en una senda que entiendo inequívocamente de

entiendo inequívoca pero ustedes tienen que presentar ya la demanda tienen que anunciar en que fecha van a presentar demanda ante el tribunal constitucional tienen hasta el nueve de marzo y todos los gobiernos que están en contra lo están haciendo y también el partido socialista obrero español que ha

al resto de fuerzas políticas poder presentarlo conjuntamente

en esta cuestión ya llevamos un año de idas y venidas porque no aceptaron ustedes la posición que tenía ya el gobierno lópez

no era una posición sectaria contra la lomce es una posición como la que ustedes en este momento tienen de profunda convicción

a cualquier sistema educativo sea vasco o no por lo tanto solo queda recurrirla

evitar y procurar paralizarla y no dando vueltas en círculos no dando vueltas en círculos

intentando avanzar lo más posible conjuntamente para eso

en el monográfico las posibles líneas argumentales de dicho recurso podrá plantearse la invasión de competencias de la comunidad autónoma de euskadi en dos aspectos esenciales como son la definición de los contenidos de las enseñanzas estándares de aprendizaje y criterios de evaluación

podrá también cuestionarse las condiciones de acceso y admisión a la formación profesional y al modelo de formación profesional en relación con el principio de igualdad de igual modo resulta cuestionable la participación de la comunidad escolar en todo caso

aquellos preceptos de la lomce que presenten objeciones de inconstitucionalidad

bien por materializar un menoscabo efectivo al derecho fundamental a la educación o por violentar principios constitucionales de singular protagonismo en el desarrollo contenido prestacional

eskerrik asko presidente andrea de manera muy breve

y también creo decir y creo que no me equivoco si digo por el peor escenario imaginado y deseado por el conjunto de esta cámara

si el gobierno vasco y lo digo porque creo que la espada de damocles que pendía de manera amenazante sobre las cabezas de los y las trabajadores sobre el mantenimiento de una parte del tejido industrial de este país en lo que tiene que ver con la planta de edesa y de geyser se ha visto por desgracia

seriamente tocada por no decir hundida con la decisión que ha tomado la mil doscientos respecto a eso nos gustaría conocer cual es la opinión de su departamento si está de acuerdo la consejera de desarrollo económico y competitividad con la valoración realizada por mil doscientos sobre el plan de viabilidad presentado por los y las trabajadoras

el criterio de viabilidad y responsabilidad debe primar en estas decisiones lo hemos comentado en más de una ocasión sobre todo para no generar falsas expectativas

no sea viable a largo plazo ese era el objetivo nuestro desde luego como gobierno

entre los trabajadores y el propio grupo mondragón entendemos que se ha trabajado de forma intensa profunda y analizando todos y cada una de las posibilidades

en manos ni de los agentes locales ni de los propios trabajadores que presentaban la propuesta si no de los administradores concursales de la situación de las marcas de potenciales futuros inversores y demás por tanto a pesar de que la noticia es la peor que nos podíamos encontrar en este momento y es cierto en eso comparto con usted tenemos que

al mayor número de personas de fagor electrodomésticos ese es el objetivo del gobierno y con el cual seguimos trabajando tanto con el propio grupo como

usted me ha oído desde esta tribuna valorar positivamente sus gestiones las gestiones de su departamento para con otras empresas lo hice con el tema holtza y no me duelen prendas en seguir reconociendo

entenderá entonces que lo que voy a hacer ahora no es una crítica destructiva el no por el no si no que es una crítica entiendo que bastante razonada

aquí hay una serie de hechos y hay una serie de declaraciones que se han hecho que cuando menos cuando menos denotarían falta de responsabilidad de tacto y de sensibilidad para con los y las trabajadoras

no se nos puede decir que no se trata de generar falsas expectativas cuando ustedes igual que el conjunto de la cámara parlamentaria pero ustedes señalaron que el plan de viabilidad tenía sentido y que le daban un valor positivo y cuando decían que en todo caso habría que operar reformas para a continuación

vayamos al asunto ustedes el veintinueve de enero

que el plan de viabilidad era un plan al que se le había dado a los trabajadores en una conversación mantenida con ellos en una reunión mantenida con ellos un valor positivo

con lo que esta cámara también ya había manifestado por acuerdo de todos los grupos parlamentarios incluido el que sujeta la acción de gobierno el partido nacionalista vasco que era

a que apoyara de forma activa y coordinada el plan de viabilidad presentado por los socios y trabajadores de edesa para el conjunto de la división de confort y

y dar cauce de desarrollo a dicho plan sin embargo

usted dice que mondragón se ha implicado se ha implicado en qué en la destrucción del tejido industrial porque claro si primero se nos dice que el plan es viable

de deshacerse de todo lo que supuso fagor le dice que no usted coge y pasa de el plan de viabilidad de los trabajadores es viable

qué valor tiene el informe técnico que entiendo soportaba la opinión de su gobierno o era una simple consideración suya

entiendo que riguroso de lo que suponía ese plan de viabilidad y ustedes le dieron el visto bueno

más acertado yo creoque o está corrigiendo a sus técnicos y entonces hay un problema en el gobierno

o se demuestra que han preferido hacer de espectadores en esta

nos hablan de crecimiento y se cierra edesa nos hablan de liderazgo y vemos que mandan otros y nos hablan
de una buena gestión y lo que vemos es que actúan únicamente de mediadores como un árbitro pero un árbitro en el que siempre ganan los mismos que son los empresarios eskerrik asko matute jauna

hitza erantzuteko mila esker señor matute nosotros siempre actuamos igual
siempre trabajamos con la implicación del gobierno siempre y cuando se impliquen los inversores decíamos y exista un plan de viabilidad y evidentemente siempre lo hacemos así y lo reitero

no es que mil doscientos manda y nosotros obedecemos ni que corrijo a mis técnicos digo lo mismo que dije en aquel momento lo reitero es decir el plan de viabilidad era un plan que podía ser sostenido siempre y cuando se dieran una serie de condiciones que había que modificar lo dije

de la implicación de una ingeniería del propio grupo mondragón sin duda usted conoce cuál es no me voy a extender en dar su nombre en este momento lo han trabajado

en la unidad de confort y eso ha fallado señor matute ese es el principal problema

que a partir de ahora no tengamos que seguir trabajando y no estoy insisto ni corrigiendo ni desdiciéndome de lo anterior simplemente digo que en este momento hemos recorrido un camino

que no vayamos a continuar trabajando porque a nosotros de verdad nos preocupa tanto como a usted esta situación